solo después de que el último árbol haya sido cortado solo después de que el último río haya sido contaminado solo después de que el último pez haya sido pescado solo después os daréis cuenta que el dinero no se puede comer eta dirua ezin da jan

berriro ere pero tranquilos porque la sociedad ya se está dando cuenta de cuál es la realidad tranquilos o preocuparos por mucho que os empeñéis en esta época de campaña y sobre todo en álava

que hay algunos sectores dentro del pnv que están en contra del fracking el partido está a favor del fracking igual que el partido popular por eso tenemos una empresa pública donde estamos destinando dinero al fracking por eso habéis intentado marear la perdiz

diciendo que lo que se quiere es explorar y no explotar cuando todo el mundo sabe

para explotar ha quedado claro también cuando habéis encargado informes

para que estudie los incentivos para la exploración y explotación de hidrocarburos exploración y explotación de hidrocarburos por qué se encarga un informe a una fundación para que estudie estos incentivos si no se quiere explotar

la postura del partido con el tema del fracking en el voto que el pnv dio a favor de la tramitación de la reforma de la ley del sector de hidrocarburos en madrid aunque aquí en gasteiz hace tiempo

y no hay nada más que ver porque lleva más de un año y medio tramitándose por los obstáculos que continuamente el partido nacionalista vasco y en este caso también de la mano del partido popular se pone

de cinco artículos y que lleva más de un año y medio tramitándose en este parlamento y es bastante triste ver como la voluntad de más de ciento tres mil personas pues queda obstaculizada por los intereses

de algunos partidos por lo tanto una petición a los dos partidos aunque solo sea porque estemos en campaña

creemos que tienen ustedes hoy una oportunidad con la propuesta no de ley

una moratoria en el tema del fraking gure eskaera oso xumea da bertan behera

gracias señora presidenta buenas tardes señorías señor lehendakari buenas tardes bildu pide solicitar al gobierno de españa que retire la nueva ley de hidrocarburos y ponga en marcha un nuevo proceso normativo con la finalidad de prohibir el fraking

no se demuestre que no es nocivo para el medio ambiente y para la salud en primer lugar decir que el gobierno de españa no tramita ninguna nueva ley el gobierno de españa está tramitando una modificación de la ley

una ley del sector de hidrocarburos primera conclusión no hay nueva ley es una modificación de una ley existente hablamos como le decía de una ley del año mil novecientos noventa y ocho después de diecisiete años pues es necesaria su modificación y su adaptación

modificación de la ley de hidrocarburos en primer lugar se pretende introducir mayor competencia y transparencia en lo que se refiere al sistema de formación de precios del sector se crea el nuevo mercado organizado del gas y se regula además

a similitud de lo que ocurre con el mercado eléctrico con esta ley con esta modificación se pretende reducir el fraude en el mercado de carburantes además se pretende garantizar mayor protección al consumidor imponiendo obligaciones de suministro

además se pretende reducir los costes para los consumidores mediante la liberalización de las inspecciones de las instalaciones

autorizando a instaladores que ya tienen la debida autorización que puedan realizar estas inspecciones hasta ahora solo

las distribuidoras se fomenta la entrada de nuevos comercializadores se crea un impuesto sobre el valor de la producción en las extracciones de petróleo de condensados y de gas se actualiza el canon de superficie ya existía el canon

este canon ya existía y se ha actualizado porque era un canon que estaba establecido en el año

se introducen además dos nuevas escalas por perforación de sondeo y adquisición de datos sísmicos y además señor maeztu esta modificación pretende que la ley de hidrocarburos sea un instrumento útil

con una red de interconexiones de gas suficientes para suministrar al resto de europa el gas procedente del magreb una actuación importantísima estratégica y que está arropada por los estados de la unión europea hace dos meses hubo una

de los estados lo manifestaron usted

torticera de una nueva ley que no es una nueva ley de las medidas que esta ley de actualización del canon puede llegar a ser

enfermiza y dice es su conclusión

que el gobierno solo pretende impulsar el fracking

quiere decir que desde el año noventa y ocho estamos impulsando el fracking no ahora si es el canon esta ley no toca las técnicas el fracking es una técnica y esta ley no la toca no tiene que ver absolutamente nada pero como le decía

y sigue ve este fantasma por todas partes y solo sabe hacer este debate

no sabe hacer otro señor

nos hacía una pregunta si es más importante el dinero o el medio ambiente pues mire yo creo que le remito al barómetro el último de las prospecciones sociológicas

pero es que el medio ambiente está en el puesto dieciséis y mire

antes que el medio ambiente y la respuesta está ahí

y ahí tiene la respuesta no la del partido popular en el barómetro la tiene

y otra cosa mire yo creo que por lo menos

y las posturas de los demás grupos le pueden gustar o no pero son todas respetables

no la comparto y manifiesto aquí los argumentos por qué no la comparto pero los términos que usted utiliza son groseros simplemente groseros

porque son distintos por lo tanto respeto a las posturas de los demás grupos que sería la primera lección que debería de haber aprendido

a continuar con el proceso de modificación de la ley del año noventa y ocho porque creemos que esta ley

las modificaciones que plantea para adaptar el sector de hidrocarburos a la realidad del siglo veintiuno y para ser un sector mucho más estratégico

lo siento usted se ha equivocado este no es un debate del fracking este es un debate de modernizar

lo entienda o no lo entienda sí que lo entiende lo que pasa que usted solo quiere venir a debatir sobre el fracking yo me quiero referir también que parece que entiendo que el grupo socialista va a apoyar esta iniciativa de eh bildu y quiero recordar un texto porque también el señor

nos recordaba algo que decía la unión europea quiero decir por todos esos fantasmas que tiene que si igual relee algo pues recupera el sosiego

legislación que la que hoy tenemos exactamente ha subrayado que no hay nada extraordinario inasumible o catastrófico en la exploración de gas no convencional y que no puede ser regulado y controlado mediante las legislaciones

europea esto le da más sosiego quién falsea usted falsea los datos que manifiesta aquí usted no sé en qué se apoya usted

está sumida por esta preocupación cuando si va al barómetro efectivamente no aparece el fracking y como le digo el medio ambiente en el número dieciséis con lo cual creo que la sociedad vasca está bastante conforme

en esta comunidad autónoma y no ve ningún peligro por lo tanto le repito que retire sus fantasmas sus obsesiones

por lo tanto nosotros como le digo vamos a apoyar la enmienda que hemos planteado

legislar aquello que facilita que tengamos un sector de hidrocarburos competitivo estratégico y que dé oportunidades a nuestro territorio al resto de españa

sí gracias presidenta muy brevemente para decir que vamos a votar en contra de la iniciativa original planteada por eh bildu es decir no vamos a pedir al gobierno de españa

nos parece que es un proyecto de ley claramente mejorable presentamos nuestros argumentos en el congreso de los diputados hace algunas semanas explicamos allí qué es lo que pensamos sobre la cuestión

es claramente mejorable pero no presentamos ninguna enmienda de totalidad y tampoco apoyamos la devolución del texto porque efectivamente pensamos que es necesario actualizar esa ley que tiene ya unos cuantos años por lo tanto esa es la posición de upyd

que es el tema sobre el que ha pretendido hablar y argumentar el señor maeztu y es el tema que le preocupa tampoco voy a decir demasiadas cosas únicamente a lo que ya hemos dicho en este parlamento sobre la cuestión por lo tanto no voy a duplicar argumentos ni debates que ya se han producido y en relación también al fracking

cuando se debata la ilp sobre la cuestión en conclusión votaremos en contra de la iniciativa de eh bildu gracias eskerrik asko maneiro jauna

bueno comenzar esta intervención diciendo que efectivamente hemos debatido en infinidad de ocasiones sobre el tema del fracking porque por mucho que se empeñe en decir que no

tiene mucho que ver con el desarrollo de la técnica del fracking en euskadi y ni más que ver la actuación que tuvo el portavoz del partido nacionalista vasco ese día en el congreso de los diputados en esta ocasión el debate llega de la mano de eh bildu después de muchas iniciativas parlamentarias y sin embargo hoy tenemos las mismas incertidumbres que al principio hoy el objeto de la iniciativa se centra en la modificación de ley de hidrocarburos que el partido popular en españa ha conseguido pasar su primer

cada vez que hablamos de este tema el partido nacionalista vasco en voz de sus portavoces en la materia

consejera del ramo siempre acaban diciéndonos lo mismo con frases que pudieran resumir la postura de los nacionalistas vascos

de nada de lo que tenga que ver con el fracking y que somos el resto los que nos empeñamos en ver fantasmas que no señora lópez de ocariz no son fantasmas

más que ya no le digo certezas pero le digo de datos informes que al menos nos hagan dudar a nosotros nos hacen dudar yo certezas claras fehacientes al cien por ciento lo tengo creo que de casi nada o de nada y desde luego de esto tampoco por lo tanto creo

por otra parte juegan siempre con la palabra exploración o explotación queriendo llevarnos a un debate como si nos quisiéramos adelantar a algo cuando estamos en esa fase cero

sabe cuál es la fase cero sabe qué es la exploración y sabe qué conllevaría la explotación por lo tanto sabemos de qué hablamos en cada momento también hablan de que mientras

que no sabemos muy bien lo que debe porque no acaban de contarlo el resto

esa es otra de las afirmaciones que hacen en esto de ocupar el tiempo en las intervenciones para acabar no diciendo nada

nos dijo lo que la señora tapia que efectivamente está en el debate ese previo

como están haciendo aquí con la ilp y efectivamente podamos saber qué es lo que quieren de esa modificación de ley que también sabemos en qué fase del proceso está y luego algo que queda muy bien

y el máximo respecto a las exigencias medioambientales es algo que se dice siempre para no acabar concluyendo en nada luego unas nuevas frases que también queda muy bien en el discurso y que yo puedo compartir

hace falta valorar y conocer para decidir eso es lo último que nos han venido diciendo

lo máximo que hemos podido saber de lo que este gobierno quiere respecto a la técnica del fracking da igual preguntar en forma de proposición no de ley

o da igual que lo hagamos en forma de pregunta escrita siempre son

pero mientras el pnv y los portavoces en la materia repiten como un mantra esta serie de afirmaciones siempre parecidas

nunca obtenemos ninguna respuesta clara todo son ambigüedades

que proceso primero de la ley que llegarán las enmiendas que bueno que ya veremos y entre tanto tenemos una campaña electoral que desde luego a mí me da igual que digan ustedes en campaña electoral pues miren sí estamos en campaña electoral va a empezar hoy a las doce de la noche

que los ciudadanos vascos sepan qué quieren sus partidos políticos

porque estemos en campaña electoral porque estamos en campaña electoral siempre

de todos los sectores durante todos los meses todas las semanas

por lo tanto llega la campaña electoral sí y sorpresa

y el señor urtaran también firman la propuesta de la plataforma que firman todos aquellos que están en contra del fracking

dice claramente impediré en las competencias que desarrolle en mi cargo el desarrollo de la técnica del fracking eso es lo que dice la propuesta

el candidato a alcalde de vitoria que votan ustedes siempre en contra de esto también y el candidato del pnv también

de qué opina el partido popular vasco y de qué opina el grupo nacionalista vasco en grupo porque lo que no puede ser es que un ayuntamiento se diga nosotros nacionalistas vasco de oion estamos contra el fracking

no mire es que aquí representamos las fuerzas autonómicas y creo que es justo que todos sepamos de qué estamos hablando en campaña electoral y en no campaña electoral pero en campaña electoral igual a más a más

y llegamos al congreso de los diputados en un gobierno con mayoría absoluta del pp que no necesitan de nada ni de nadie no hay más que ver lo que están haciendo

para votar algo que si hubieran querido pasar de rondón no hubiera hecho falta y votan a favor de la toma en consideración de una ley que va en contra de eso que dice la señora tapia de interés público aval técnico

sin ningún tipo de necesidad porque no hace falta que sumen con nadie pero con todo esto tampoco podemos tener ningún tipo de duda pues bueno ya no los explicará el señor del pnv cuando baja y lo cierto es que venimos repitiendo una y otra vez argumentos una y otra vez iniciativas

pero ahora con un punto añadido grupos que presentan enmiendas y grupos que reciban enmiendas justo antes del debate no sé si es porque no terminan los debates ellos o no sé si es porque cambiamos de opinión porque señor maneiro su enmienda que retiró dentro del tiempo perfectamente decía textualmente lo mismo que proponía el señor maeztu que se retirara la ley de hidrocarburos

el criterio sobre una ley no se decide en un mes digo no sé

puede ser que se equivocaban a poner retirar y querían poner afianzar no lo sé pero lo que está claro es que ustedes tenían una opinión en el momento que bildu presentó la iniciativa

eso es lo que creo por lo tanto repetimos y repetimos instamos en el proceso este de la ilp

no sé que la modificación del estatuto de autonomía o que del reglamento de esta propia cámara una ilp que tiene tres folios tres quiero decir que nos lo sabemos de memoria los portavoces en la materia

en dos años en fin y aquí seguimos mareando la perdiz

que queríamos que llegaran las municipales con las ideas claras para que los ciudadanos supieran qué votaba cada uno a la hora de hablar del fracking porque

pero lo que no se puede criticar señores del pnv es a quien gobierna en españa por ahogar a las renovables y traer aquí una retahíla de comparecencias para poner al señor mariano rajoy

para acabar apoyando la modificación de ley de hidrocarburos porque lo veremos acabarán apoyando la modificación de ley de hidrocarburos no se puede atacar al gobierno central todo el día por ser ese estado opresor que no nos deja desarrollar las competencias y cuando podemos desarrollar algo que está en nuestras manos

alargamos y alargamos y alargamos para que luego nunca llegue el debate no se puede votar a favor del fracking

lo explicarán lo veremos es lo que el grupo nacionalista vasco hace no se pueden atacar los compromisos de una plataforma como fracking ez y acabar presentando en municipios el texto literal que te da la plataforma y que un partido político se hace eco

no se puede definir un gobierno como el ejemplo de la transparencia y que seis años después no tenemos ni idea es verdad que ustedes

entonces estamos en una situación que empieza a ser surrealista los que están en contra del fracking firman lo que está a favor del fracking

para una ley que no sabemos muy bien qué quiere porque según usted no tiene nada que ver con el fracking resulta que ahora esto no es importante porque es el número dieciséis en el barómetro

carguémonos el medio ambiente pues a ver si nos ponemos al día en españa en temas de paro de corrupción

pero porque el medio ambiente esté en el número dieciséis no quiere decir que nos dé igual

y ser capaces de dar respuestas y señora lópez de ocariz comparto que probablemente haya que modificar la ley esta y otras que vienen de años y años y años

qué pretende esa modificación de ley y con quién se va a hacer la modificación de ley y si usted se lee el diario de sesiones del día del debate en el congreso se ve claramente

porque ustedes pueden decir claramente que estamos en la fase cero que luego llegará la exploración que no sabemos si llegará la explotación pero cuando cualquier político

a debatir la ley de vivienda la ley municipal o la ley de víctimas del terrorismo tú tienes una predisposición o un tipo de aptitud sobre qué quieres de ese proyecto de ley

y hay cosas que lees y dices bueno pues por aquí puede ir porque todo tiene parte de ideología porque aquí no estamos jugando a un circo estamos haciendo política y yo sé perfectamente qué pretenden estos señores con el fracking y sé lo que pretenden ustedes
pero es que ustedes mire no me rojo andrea amaitzen joan termino señora presidenta

está jugando a lo que pretende que es el despiste entonces creo que a ver si por fin ustedes nos pueden explicar qué es lo que pretenden hacer pero tal y como se puede leer en una no encuentro ahora exactamente la fotocopia el ministro soria dijo claramente que a través de la ley de hidrocarburos

al fracking ya que era algo que se tenía que desarrollar dado la crisis económica en la que

arratsalde on guztioi eskerrik asko legebiltzarburu andrea bien qué ha votado el pnv en madrid lógicamente modificar y que siga adelante la modificación de esta ley de hidrocarburos de mil novecientos noventa y ocho bien a qué hemos venido hoy aquí

los incentivos a la extracción de todo tipo de hidrocarburos no sea más que un punto muy concreto de esa ley de hidrocarburos

en el plazo de enmiendas ustedes pueden presentar lo que les dé la gana no tienen ningún problema hablamos de aquí

y ha escuchado mareando con la ilp poniendo obstáculos

vamos a ver sobre cómo esta ley que pide una prohibición total

esta proposición de ley para investigar y explotar estos hidrocarburos resulta que está tumbada por el constitucional tenemos tres comunidades autónomas que lo tienen recogido

por favor lo que hay que hacer es trabajar con rigor y eso es lo que hemos pedido

tenemos cuarenta y dos leyes tramitando en estos momentos o ya se han tramitado solamente en esta legislatura esta es la especial esta es la que tenemos que correr porque porque sino el señor maeztu y la señora rojo no salen en la foto

de ver quién es el que mejor posturea y entonces teníamos que tener ya la ley hecha no señor solamente

este informe de salud pública que se presenta en diciembre del dos mil catorce

en septiembre del dos mil doce luego esto es un tema para tratarlo con mucho rigor y respecto al criterio del partido nacionalista vasco con esta ley

el gobierno dejamos claramente un estudio de evaluación de impacto ambiental y dieciséis pozos lo que hoy se llama el estudio de evaluación íntegra todo junto

pidió ampliación de documentación cuando entraron que le dijeron no oiga usted no me pida documentación de dieciséis pozos nos quedamos con uno

empiezan pidiendo otro pidiendo otro y acabamos en nueve y ha tenido que ser este gobierno el que ha vuelto a reconducir todo y ha vuelto a la posición inicial

y estábamos tan perdidos que esa propia sociedad esta sociedad vasca castigó a ese gobierno

la exclusión de la licencia social no había esa licencia social y por qué porque ustedes venían ya con un proceso bastante falto de transparencia

del famoso programa electoral o el programa de gobierno del partido socialista que hubo que constar quince documentos pero empezamos con once luego con trece luego al final acabamos con quince quince documentos para formar un único programa de gobierno luego llegamos con el boe

de lo que es de los de investigación de hidrocarburos y acabamos en lo mismo

pues qué va a pensar la sociedad ojo y precaución qué le dijimos nosotros y no tengo que volver a sacar el diario de sesiones el mismo día

pues que se le cayó la cantina de la leche y adiós el cuento de la lechera porque había que hacer para extraer todo eso había que hacer cientos de pozos qué va a opinar la sociedad vasca lógicamente tiene mas miedo muchísimo miedo y la percepción de ese riesgo es real y que ha hecho el pnv pues esa percepción de riesgo lógicamente

pues que el primer ayuntamiento de aquí tenga que ser el de cuartango y que no sea de ellos de eh bildu por qué

pero como todo postureo tiene su doble cara tiene cara y cruz y es así

eskerrik asko legebiltzar buru anderea con esta ley se pretende

con esta ley lo que se pretende es poner una alfombra roja al fracking

titulaba rajoy crea un impuesto para vencer la oposición social a las prospecciones

el gobierno busca vencer la resistencia de los contrarios al fracking el país están enfermos señora ocariz están enfermos

la agencia una de las agencias más seguidas también en el estado español en concreto la norma plantea la prohibición la fractura hidráulica

de hidrocarburos donde se recogen incentivos fiscales para ayuntamientos y comunidades

enfermos por cierto está muy bien salir aquí pedir respeto y llamar enfermo a un parlamentario

cuando sabe perfectamente que esta ley y porque lo dicen los periódicos que han seguido la tramitación de esta ley es

con dinero con impuestos que existe hoy en día

ustedes nos piden a nosotros mucho mayor rigor rigor en que eh bildu defiende lo mismo en el parlamento de gasteiz que oion en subijana o en cuartango

no cuál es la empresa que más permisos tiene en estos momentos

shesa una empresa cien por cien pública en manos del gobierno vasco

podría renunciar a todos los permisos qué está firmando

en subijana en cuartango o el candidato a la alcaldía de vitoria

por evitar el fracking rigor para quien para el que dice una cosa desde esta tribuna y hace otra cosa

por favor señor carro será campaña estaremos en precampaña pero llevamos defendiendo lo mismo con el fracking

cinco años en esta cámara lo mismo

no por lo tanto haber para quien es el rigor eta bukatuko dut esanez berriro ere sekulako aukera daukazuela

sí gracias señora presidenta señor maeztu

a cuántos cánones de ocupación de suelo han renunciado los ayuntamientos de bildu cánones de antenas de eólicas de canteras de extracciones a cuántos

a ninguno de qué habla realmente de qué está hablando si usted para traer aquí el fracking ha cogido esta modificación de ley

de qué me está hablando de qué me está hablando señora rojo por un momento me ha parecido que opositaba usted

francamente política energética del partido socialista yo puedo hablar de lo que usted ha dicho en esta cámara y lo que el gobierno lópez

en dos mil once el gobierno lópez aprobó la estrategia energética de euskadi dos mil veinte la recuerda esa que se han olvidado de repente de ella

y competitividad del suministro del sistema gasista le suena segundo punto apoyar la creación de un mercado organizado de gas con la participación activa de la comunidad autónoma del país vasco

en la estrategia esto es lo que esta modificación hace no sé si en el dos mil once a ustedes les importaba y hoy ya no

me confunde es la política del péndulo cuando gobierno estoy en un lado una postura y cuando no gobierno estoy en la otra

de un plumazo no

señora rojo esto paralelo en el mismo tiempo a la foto qué político ha ido a hacerse la foto a dallas con los pozos qué gobierno quién ha ido

del partido nacionalista vasco ni el gobierno de españa fue el señor lópez le faltó tiempo para ir

qué decía decía más cosas euskadi aspira a convertirse en una potencia gasística europea con la colaboración de dos empresas de estados unidos

ustedes están en contra pero aquí les vestía mucho el fondo y la foto el ejecutivo autónomo cree que hay reservas para cubrir el consumo durante sesenta años bueno esta era su política energética cuando gobernaba ahora está en otra cosa

eso lo repitieron por activa y por pasiva en esta cámara

viabilidad técnica viabilidad económica y viabilidad medioambiental en tercer lugar porque primero era la técnica

y tercero era medioambiental y eso lo repitieron hasta la extenuación cuáles son los principios que los demás grupos presentamos aquí en una

no se quiso sumar respeto medioambiental conocimiento científico mejores técnicas y beneficios para la sociedad eso diferencia su política energética de otros

verdad que ustedes cuando están en el gobierno están en unas cosas ahora nos traen aquí el medio ambiente oiga pero señora rojo que primero

segundo ponían la parte económica y tercero la parte medioambiental

que no nos sirve que esto ya tiene una larga trayectoria reniega de la política del señor lópez reniega de la política como lo hizo en otro debate

cuál es su política energética es que no nos ha dicho no nos dice cuál es su política energética critica la del resto y la suya cuál es era la del señor lópez la del señor

socialistas para criticar todo lo de los gobiernos

desde luego que sus posiciones en esta cámara si de alguna se puede decir que son contradictorias son las del grupo socialista que en cuanto dejó el gobierno

no aprobamos este tipo de técnicas y eso es el argumento del alcalde de vitoria para proteger la zona de los montes de vitoria que lo ha explicado muchas veces lo que pasa es que usted quiere oír

gracias presidenta muy poco tiempo para muchas cosas señor carro efectivamente hay tres

sabiendo donde está el error de cada uno de los textos usted cree que seremos capaces de encontrar

yo le digo que el partido socialista sí ustedes no será su problema eso una

en una actitud absolutamente vergonzante de quien le está apretando el zapato cuando empieza la campaña electoral porque no quieren decir dónde para no decir lo que piensa señora lópez de ocariz no se dé por aludida estoy con carro

usted ha venido aquí durante cinco minutos de diez para no decir nada le vuelvo a repetir la pregunta sí o no punto

que si lópez hizo que si el casco que si el informe que si no sé qué que no

partido nacionalista vasco sí o no eso es lo que quiere saber el ciudadano porque podemos irnos a la época de franco de que defendían aquellos respecto a no sé qué

marear falsear y mentir al ciudadano mientras aquí apoyan al fracking urtaran vota no al fracking respuesta señora lópez de ocariz

pero usted viene aquí a darnos lecciones de educación clase

de bildu que creo que no pero desde luego usted

puede venir usted a ser telonera de pnv por ejemplo

como gobiernan en españa y estos les hacen falta de vez en cuando han dado la vuelta para acabar pactando con el partido nacionalista vasco por ejemplo le voy a decir y entonces cuál es mi modo energético mire es que no hemos venido hablar del modelo energético del pse que se lo puedo explicar cuando quiera

de ley de hidrocarburos que propone el gobierno rajoy atenta contra el medio ambiente de euskadi

que en aquel momento miró para otro lado y entonces usted dice no es que ustedes decían tal yo le digo una cosa hace no me acuerdo creo que no llega a un año cuando esta misma parlamentaria

dijo que después de todo lo que sabíamos hasta ahora de lo que sabíamos en aquel momento el partido socialista de euskadi hacia una modificación de lo que había estado defendiendo porque entendemos que no se puede hacer política de espaldas a los ciudadanos eso es lo que dijimos

muchos debates pero ha llegado un momento en el que usted no saben salir aquí si no hablan del señor lópez por supuesto

y hoy sale de rondón el señor sebastián y si usted escuchara los debates

dije que en el permiso génesis que en aquel momento debatíamos en aquel momento aquella decisión tomada

que quiere decir que eso está en contra de toda la política energética del señor sebastián no desde luego la política energética no es la de cañete la que se parece a la que defiende el partido socialista eso se lo digo desde ahora y de quienes defienden las prospecciones en el mar de canarias tampoco

tampoco y de quienes hacen que quieren hacer pactos en las juntas generales para pactos eólicos para luego tumbarlos cuando viene al parlamento vasco tampoco y usted

es quien ha pactado con el partido nacionalista vasco para que una ilp que podría estar debatida

para que los ciudadanos supieran de qué estábamos hablando si no es terminado el dictamen sí las enmiendas registradas usted ha pactado con estos señores alargar y alargar

javier maroto está en contra y en el fondo los

porque el señor maroto dice no quiero energía nuclear y vota que no no quiero fracking y vota que no y estos señores pues en el fondo

bajando a la tribuna a marear para no decir nada

es que desde luego yo tengo un modelo energético claro en esa ponencia se acuerda usted que creamos que también está alargar alargar y alargar para que esa ponencia nunca termine

hombre mire aquí sabemos todos claros que es lo que hay y señor carro le repito

sí o no es lo único que quieren saber los ciudadanos vascos sí o no al fracking porque hoy van a decir el mareo

y el lehendakari mirando para otro lado seguirán los proyectos del fracking de la mano del partido popular en madrid

o en nanclares el partido socialista defiende lo que defiende en todos los municipios

y ustedes que van tanto de partido de país los vascos de lo vasco los que lo defendemos todo

por deferencia señora rojo hablaré primero con el señor maeztu ya que ha presentado la iniciativa y luego ya le dedicaré unos minutos a usted

rigor pero no me negará que

a ustedes no le ha venido bien para que cuando el tribunal constitucional da su opinión sobre la ley catalana

aprovecha esa línea es lo que queremos todos mejorar esa ley y se puede mejorar pues claro y usted mismo lo reconoció luego una cosa es hacer y otra cosa es decir porque bildu también tiene cara y cruz y no solamente en esa historia

están llenos de ejemplos

qué ha pasado con los presupuestos de todos los ayuntamientos guipuzcoanos que han tenido que aprobar y mantener el real decreto ahí y no pasarse el déficit por qué porque ustedes dicen algo y pían algo aquí de boca

y hablan mucho de sostenibilidad y me acuerdo aquí cuando quedaron

y todos como locos a sacarle la foto y cuando empiezan a indagar sobre la sostenibilidad resulta que sí que es que sí que ha venido cuatro kilómetros y medio desde el portal de gamarra hasta aquí

cuatro kilómetros y medio cuatro kilómetros y medio vino esquiando desde el portal de gamarra y sino que lo reconozca él vino pero qué ocurre
vino esquiando al parlamento isiltasuna mesedez y a qué voy a llegar

es que tienen mucha sostenibilidad pero también tiene un coche con hidrocarburos como todos e hizo en vez de cuatro coma cinco hizo cincuenta y cuatro kilómetros desde ermua hasta el portal de gamarra en coche

pues que hay que buscar energía para todos señores luego una de cal y otra de arena esa es la realidad

bueno y no les cuento ya lo de anoeta lo de anoeta lo dejo eso de que anoeta no y ahora anoeta sí por qué
porque estaremos en elecciones igual no eh bildu

usted no debe de estar muy atenta yo cuando estuve el veintiocho de marzo en la korrika

de la ilp y ya me dijo qué enmiendas iba a meter

si la ciudadanía lo tiene bastante claro de qué es lo que hace el pnv y qué es lo que no hace usted sin embargo sí que tendría que tener

creo que usted sí que conoce a este señor se llama y esto ha sido del once de marzo del dos mil quince

e insiste que con riesgo medioambiental cero desaprovechar sesenta años de gas no sé quién está en disposición de hacerlo pues este ya sabe qué esto no ha sido el partido nacionalista vasco esto ha sido patxi lópez con lo cual el lío en casa es usted aquí lo tenemos bastante claro desde que nos estalló esto en el dos mil once mucha prudencia control público de los recursos sí

investigación sí pero no a cualquier precio y en esa línea estamos

aquí se nos sacude es lo que nos toca vale lo aceptamos pero seguimos trabajando con rigor y con respeto a madrid nosotros llevamos ya más de treinta años trabajando por aquí por el país vasco usted probablemente o sus antecedentes o sus anteriores sí

de ese grupo creo que no estaba a otras cosas eskerrik asko eskerrik asko carro jauna eztabaida amaituta

llevan años experimentando importantes variaciones en su localización seguridad riesgo costes

la pequeña en el tiempo pero dramática en consecuencias historia de estos últimos años de cajas y bancos ha derivado en escándalos deterioros patrimoniales destrucción de empleo cierres de negocios desahucios intereses abusivos ruinas

a muchísimos ciudadanos y ciudadanas los sellos las subordinadas las preferentes determinadas hipotecas la cláusula suelo son

de excesos y abusos comerciales operados en cajas y bancos en innumerables casos de estos productos ha quedado demostrado que se ha jugado

en otros ha quedado acreditado que se ha abusado de la confianza en otros de una información insuficiente en cualquier caso los perdedores siempre han sido los mismos los consumidores en este parlamento hemos tratado en muchas sesiones estos problemas y en diversas ocasiones ha tenido que intervenir la política

y para tratar de paliar algunas de las consecuencias de estos excesos y abusos la justicia también ha actuado y a fecha de hoy son muchas las sentencias que han fallado en defensa del consumidor legislaciones por un lado y sentencias por otro han ido reparando y corriendo parte de esta dramática situación

en la actualidad existen productos difícilmente interpretables comprensibles y evaluables para los clientes llegando a desconocer el alcance de lo que consumen o adquieren a diario en las oficinas de las entidades financieras

si es alto medio o bajo productos sobre los que desconocen cuáles son sus ventajas cuánto les va a reportar cómo y de qué manera lo pueden cancelar

en las entidades de la competencia las entidades financieras venden muchos seguros

hasta que tienen un siniestro también venden fondos de inversión de los que se desconocen su rentabilidad

hasta que te pasan la factura venden operaciones de las que no se sabe la comisión hasta que hay que pagarla cobran comisiones por descubiertos en ocasiones injustamente

cada día restringen más el operativo y la disponibilidad para gestiones de recibos y para otro tipo de atenciones a los usuarios y además que se sepa a fecha de hoy

estos y otros problemas requieren nuestra consideración y también un tratamiento según el departamento de conducta de mercado y reclamaciones del banco de españa

las reclamaciones aumentaron un ciento cuarenta y dos por ciento respecto a dos mil doce buena parte de estas reclamaciones

aún así en muchas de ellas las entidades financieras no quisieron atenderlas

la mayoría de usuarios de banca lo que más solicitan es que se les vendan productos fáciles de entender

parece que todavía estamos lejos de este objetivo porque siguen proliferando productos vinculados a múltiples condiciones con limitaciones y comisiones o semiocultas en un estudio realizado por adicae sobre la educación financiera uno de los datos más relevantes es que el setenta por ciento de los usuarios consultados quiere más formación porque desean tener más seguridad

ya que temen que les cuelen cláusulas abusivas y productos tóxicos las entidades financieras son muy conscientes de esta situación y para curarse en salud

escándalos protestas quejas y judicialización de casos han decidido tratar de transferir toda responsabilidad al consumidor o dejar que el consumidor se dé de bruces con esa realidad dicho de otra forma las entidades financieras han decido autoprotegerse pero de la forma en que lo están haciendo no está nada claro más bien al contrario

de papeles al consumidor y de recabar su firma garantice con seguridad que el consumidor sepa qué está adquiriendo

o qué servidumbres y costes tienen los servicios y productos que le ofertan la abundancia de papel supuestamente informativo y el requerimiento de firma del consumidor

para tratar de que las entidades financieras no se responsabilicen ante la justicia de lo que venden pero no queda claro que sirva para mucho más el exceso de información

de ahí que la política que debe velar por el interés colectivo sea capaz de construir y ofrecer al conjunto de la ciudadanía a la parte más vulnerable en esta relación comercial herramientas de conocimiento y defensa en la adquisición de estos servicios y productos en la actualidad hay entidades financieras que

o de otra naturaleza instruyen a sus empleados para que no pasen demasiado tiempo

a los clientes como dicen algunos que gestionan recursos humanos no se trata de actuar como asesor del cliente sino como vendedor que el cliente compre y firme que ya tiene los papeles la información y ahí el trabajo sin embargo cualquier profesional honesto del gremio sabe y así lo manifiesta cuando se le pregunta que los consumidores según que productos

de la confianza del gestor de la entidad financiera para decantarse por un producto y tener tranquilidad sobre lo que está adquiriendo

de anular asesoramiento de calidad por información a peso

y con el objetivo de evitar que se repitan en el futuro los socialistas hemos decidido traer a este parlamento esta iniciativa para consideración de todos ustedes una iniciativa que se sustenta en tres razonamientos más el primero

que de una u otra manera afecta a la mayoría de la ciudadanía el segundo porque entidades financieras semipúblicas o privadas

sujetas a leyes hechas por instituciones públicas

entre otros por lo tanto hechas desde la política cuyo funcionamiento y resultados nos implica y nos exige observar los fallos y problemas que genere

para asistir y rescatar a buena parte de las entidades financieras visto y sufrido lo que nos está costando

al interés ciudadano si la política nacional e internacional ha salido en defensa del sector financiero con ayudas económicas multimillónarias trasladando su coste a toda la ciudadanía sin excepción

estratégico muy superior al de la sanidad la educación el empleo o las políticas sociales

en el ámbito de nuestras competencias quien debe garantizar en última instancia la protección de los consumidores son las leyes y los organismos

para tomar mejores decisiones pero ni sustituye ni complementa los derechos de los usuarios y la correcta regulación del sistema financiero mientras las entidades financieras están desarrollando una estrategia para que la responsabilidad de que no se cometan abusos recaiga en el consumidor al cual se le carga la obligación

la realidad es que la relación entre la entidad financiera y el consumidor es profundamente desigual al consumidor casi siempre se le ofertan contratos preestablecidos solo por la entidad financiera sin ningún margen de negociación por lo que la relación se convierte en una simple adhesión

que fija la entidad con toda seguridad para mediar intervenir y resolver en favor de la transparencia y el equilibrio entre cajas y bancos y usuarios

establecer más controles y sancionar con más contundencia los abusos en este itinerario también debemos sacar más provecho de las herramientas públicas que ya existen en euskadi disponemos de un instituto vasco de consumo kontsumobide

en las transacciones económicas mediante información formación y protección de las personas consumidoras y usuarias ante la compra de productos y servicios

y procedimientos que permitan a las personas elegir mejor los productos y servicios más adecuados

y exigencias sin duda alguna en el ranking de necesidad de información formación y protección está en primer lugar los productos y servicios de las entidades financieras señorías en este escenario resulta

que kontsumobide intervenga el interés que ha suscitado esta iniciativa en esta cámara es evidente partido nacionalista vasco y bildu han presentado enmiendas que si bien aportan matices y algún aspecto nuevo en el núcleo principal de nuestra iniciativa muestran

con el objetivo finalmente hemos hecho una transacción con el partido nacionalista vasco que espero que tenga más apoyos que abre el plazo

el trabajo de kontsumobide lo amplía un poco ante

con las asociaciones de personas consumidoras de euskadi y a la información con otros trabajos comparativos por lo tanto espero que

la ciudadanía vasca los usuarios de los productos financieros de los servicios y los productos financieros puedan disponer de más protección de más defensa de mas información y de más formación para que la transacción con esos productos y servicios sea

con cantidad de situaciones anómalas como viene ocurriendo en los últimos años muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

aurretik y es que como digo corría

el feliz día del trece de marzo del dos mil catorce y digo feliz porque fue una iniciativa

del resto de los grupos cosa que no había sucedido hasta entonces y que posiblemente sea difícil que vuelva a suceder en el que en el punto cuarto de la propuesta

un punto que decía tal que así el parlamento vasco insta a kontsumobide a realizar un listado de la reclamaciones recibidas en kontsumobide en relación con las practicas fraudulentas que el sistema financiero haya realizado

a este parlamento y o articular con las asociaciones de consumidores un sistema de asesoramiento sobre los diferentes productos financieros que permita

ante toda la contratación de estos el conocimiento exacto de lo que va a adquirir y los beneficios y riesgos

ahora mismo a la enmienda que se nos presenta a la enmienda transada lo que podemos ver es que por un lado el primero de los puntos solo aporta de nuevo y nos parece algo interesante no le quitamos valor

se quedaba en kontsumobide y por otro lado lo que seria la aportación del partido nacionalista vasco ya se decía y ya estaba aprobado el tres de marzo del dos mil catorce con lo cual no hay nada nuevo

en un debate bastante interesante y vehemente sobre la especulación bancaria hoy quizás no sea el día

contundentemente al sector de la banca comercial y de decir que son los causantes de miseria

que si hay un sector económico que en su actividad tiene las manos manchadas ese es el de la banca comercial en eso estamos de acuerdo

de europa de euskal herria y para los cuales poco o nada importan estas instituciones ni ningunas otras se creen por encima de los pueblos

deponen gobiernos democráticos y en definitiva mandan mucho pero mandan mucho porque se le ha dejado y porque se les ha permitido que manden mucho

informazio gehitzea du helburu gure iritziz oso garrantzitsua den informazioa pedimos que los bancos nos digan en qué van a invertir nuestro dinero para poder pagar los interés armas desahucios ahogar a países

financiar a empresas que expolian riquezas de otros pueblos apoyar financieramente golpes de estado para favorecer gobiernos de sátrapas y corruptos

sus beneficios nos imaginamos que no serian tan claros en caso de que nos fuesen a decirlo pero sin embargo organizaciones internacionales sí lo han hecho y sí lo han dicho por lo menos a la financiación que realizan los principales bancos del estado español en cuestión de empresas armamentísticas algunos datos que me gustaría darles son todos los bancos del diferencial español poseen inversiones en producción armamentística en dos mil doce

considerablemente su participación en el año dos mil trece bbva con un tres mil setecientos millónes de euros acumulados en prestamos a empresas de armas y banco santander

del estado español la opacidad en las cuentas de las empresas del ibex treinta y cinco desdibuja la inversión real de la banca

conceder financiación a la industria bélica

las ocho entidades acumulan ciento cuarenta y dos sociedades en paraísos fiscales esto no lo digo yo

literalmente el presente informe analiza detalladamente las relaciones económicas y financieras existentes entre los grupos bancarios españoles incluidas sus filiales y los productores de armas controvertidas desde enero dos mil seis sobre la base de un listado elaborado por el banco de españa

un análisis de los ochenta grupos bancarios que tienen sede en el estado español incluyendo a sus filiales en el país y en el extranjero

es conocida y cuando hablo de armas controvertidas son municiones de racimo armas nucleares minas antipersonas armas de uranio empobrecido armas biológicas y químicas y continúa diciendo el informe

en manos de fondos de inversión gestionados por bancos españoles y por sus filiales

por parte de estas compañías desde enero del dos mil seis finalmente hemos identificado todos los prestamos que los bancos españoles han concedido a las compañías

identificado catorce bancos españoles que han participado en la financiación de un total de diecinueve productores de armas controvertidas hay que recordar y vuelvo a decirlo que las armas controvertidas se definen como

minas terrestres armas de uranio empobrecido armas nucleares armas biológicas y armas químicas las conclusiones que se desprenden de ese informe y que no las digo yo son el banco español que mantiene una mayor actividad de financiación de productores de armas controvertidas es el bbva los fondos de inversión gestionados por el bbva poseen acciones

bbva ha concedido prestamos a ocho compañías desde principios del dos mil seis y ha ayudado a tres compañías en la emisión de bonos

a una empresa en la emisión de acciones segunda conclusión el banco español que ostenta el segundo lugar en la financiación a productores de armas controvertidas es santander

santander ha concedido prestamos a siete compañías y ha ayudado a tres compañías en la emisión de bonos la tercera de las conclusiones de los demás bancos españoles solo uno ha concedido un prestamo a un productor de armas controvertidas que es bankia

la cuarta de las conclusiones y última otros bancos españoles cuyos fondos de inversión poseen acciones de productores de armas controvertidas son bankia banco madrid banca march banco popular banco sabadell bankinter cataluña caixa finanduero ibercaja y mapfre

de ocho productores diferentes de armas controvertidas el siguiente es el banco sabadell con acciones en siete productoras de armas es de donde provienen los intereses porque aparte de los riesgos y de los intereses que puede tener un producto financiero creemos por lo menos desde euskal herria bildu que es importante

y no creo que en esta propuesta que se nos ha presentado por parte del partido socialista de euskadi

no pudiese ser aceptado y sinceramente creemos que era más importante que cada uno de los aquí presentes tuviesen que explicar por qué no podían aceptar que este punto se pueda aclarar y pueda estar presente en el informe que ustedes piden hauek dira erakunde

que se haga saber a la ciudadanía de dónde obtienen los beneficios de la especulación que se sepa que hay entidades financieras éticas

de triodos y fiare representantes de la banca ética o por lo menos de una banca más ética

bancos y cajas y por ello debemos conocer comparar y ser libres para elegir si queremos financiar con nuestro dinero las tropelías de esos banqueros la enmienda que se ha transado se queda donde ya estábamos y es así se queda en lo que ya estaba probado

comprendo que el partido nacionalista vasco no quiera entrar a atacar a los bancos

de sus electores los banqueros no entendemos que otros grupos que dicen ser progresistas no entren a un acuerdo con nosotros y con nosotras

en votación abren el camino del cambio hoy vuelven ustedes a quedarse atrás y seguimos donde

para empezar no sé vengo a hacer electoralismo porque

nos van a votar y por tanto he venido aquí a conseguir esos cinco votos

cinco banqueros para nosotros es fundamental andamos ahí en esa

nosotros venimos a defender a las personas consumidoras por supuesto estamos aquí entre otras cosas para eso y no porque sean votantes sino porque son personas

y por tanto no voy a abundar en ella no obstante sí creo que merece la pena aclarar algunas cosas insisto de que soy firme defensor de la transacción de la que hemos llegado

una de las misiones de kontsumobide es llevar a cabo estudios promover para evaluar las dinámicas de consumo para fijar los instrumentos etcétera el problema es que llevamos esta legislatura que cualquier grupo parlamentario coge esa frase

y le añaden hacer un estudio a kontsumobide entonces llevamos aquí

y tener a kontsumobide estresado permanentemente con todos los técnicos estudiando esta gama de conceptos

y no solo eso sino que además habla de promover por tanto por eso hemos metido la transacción promover es no hacer estudios directamente si no a través de otros y luego

el catálogo de cosas y de precios que hay dinámica de consumo es otra cosa mucho más amplia que esa que no se soluciona con ese catálogo que ni siquiera sabemos a cuántos ciudadanos pueda llegar

miren porque todo esto es una fuente inagotable de datos lo mismo podemos

calzoncillos bóxer que sobre la patata kennebec que en todos los ultramarinos vascos

pero insisto no vamos a conseguir gran cosa hoy nos tocan los productos y servicios bancarios en todas las instituciones financieras que operan en euskadi claro y seguramente con continuidad que las cosas van cambiando van evolucionando cambian los precios cambian los beneficios yo

yo solo una pregunta a pesar de que hemos insisto vamos a hacerlo y hemos pedido que se haga pero me gustaría que reflexionemos a futuro sobre este tipo de estudios que estamos encargando porque con esto realmente estamos ayudando a los ciudadanos y ciudadanas de euskadi realmente les ayudamos con estos estudios

para contextualizar las cosas un asesoramiento financiero a las personas consumidoras vascas

como era incapaz de abordar inicialmente aquella tarea con sus recursos propios subcontrató con la upv un servicio de asesoramiento financiero se

y se personaron diecinueve personas diecinueve de las diecinueve personas que se personaron para que se les asesorara once

relativamente sencillas y el propio personal de kontsumobide lo solucionó los otros ocho fueron desviados a la upv

una vez terminadas las consultas de los ocho la upv se reunió con kontsumobide y les explicó que más

el pleno de este parlamento en su soberanía tomó una decisión de encargarle a kontsumobide un estudio de asesoría

sobre sus impuestos porque en el fondo

de distintos temas de consumo solo un seis coma ocho por ciento lo fueron de

seiscientos noventa y cinco o sea ni un siete por ciento fueron reclamaciones de bancos y cajas y en concreto un diecisiete por ciento de ellas de cláusulas suelo y si ya vamos al colmo a los expedientes sancionadores se abrieron ciento sesenta de los cuales quince un nueve por ciento fueron de bancos y cajas

esta es la dimensión del problema de preocupación de bancos y cajas en los ciudadanos vascos y es que además y además agradezco que se haya aceptado en la transacción hay cantidad de información lo mismo que ocurrió en el debate que tuvimos no hace mucho sobre las gasolinas hay una información exhaustiva en las páginas web en internet exhaustiva y fiable de hecho

una asociación de consumidores tiene una web potente un comparador financiero pero es que están la web de expansión la web de bankimia el busconómico comparativadebancoscom rankiacom

están ahí y se actualizan a un costo cero para los ciudadanos vascos por eso también hemos transaccionado

de consumidores de hecho este año se acaba de firmar creo que la semana pasada si no esta semana

se ha conveniado la realización del estudio que hoy estamos pidiendo aquí el análisis comparativo de ofertas de servicios

si lo hemos transaccionado es para mostrar caminos que van más allá de encargar trabajos a kontsumobide y esperamos y por eso insisto en el tema que sean caminos a elegir en un futuro

me voy a referir muy someramente porque no merece mucho la pena a la solicitud compleja sobre el uso de beneficios lugares de la inversión a ver

todos los de kontsumobide o las empresas que les contratemos como locos o podemos comprar cada uno una acción

y preguntar allá es otra posibilidad seguramente más barata y además nos vendrían beneficios de la compra de acciones porque

revistas porno qué beneficios tiene dónde invierte esos beneficios para qué usa esos beneficios

o que hace un cuarto de baño se dice también en qué sectores se invierte por qué no le décimos porque además cuando uno vende seis revistas porno si gana algo de dinero lo mete en el banco y dónde va el dinero de ese banco claro en qué banco lo ha metido usted en el sabadell buf ese compra granadas de mano está usted penado no le voy a comprar revistas porno claro podemos irle dando vueltas al sistema

sí les puedo decir en cualquier caso que me ha costado entender algunas cosas de alguna enmienda y la idea es que en principio

en algún sitio creo que está mal expresado lo he comentado esta mañana con el señor lópez de munain

puede ser en definitiva en cualquier caso también puede ocurrir que me haya ocurrido como dijo eduardo galeano

sí queremos defender a los ciudadanos queremos informarles queremos aprovechar la información múltiple que por ahí circula sin obstruir los servicios técnicos de kontsumobide porque también defender a los ciudadanos es intentar gestionar los recursos públicos

más económicos posibles y también estamos de acuerdo en aprovechar las asociaciones de consumidores para hacer este tipo de estudios de otros temas insisto prefiero no seguir

si puedes controlar la información puedes controlar a la gente que es lo que yo creo que a muchos les gusta

sí únicamente para decir que votaré a favor de la transaccional

de la bondad de la enmienda transaccional a la que han llegado y como no podía ser de otra manera nosotros también estamos a favor de los consumidores

incluso aunque estemos en periodo electoral y no nos vaya a votar ni los banqueros ni los consumidores

dicho esto yo solo quiero decir una cosa hay a veces iniciativas muy bien intencionadas que pueden conseguir lo contrario y voy a ver si me explico está muy bien que kontsumobide establezca un ranking de cuáles son los productos financieros y de entidad financiera

ese banco que está en el primer ranking lo sube y ya no es lo mismo

a esa entidad financiera y resulta que lo mejor en ese momento ya es la última entonces yo casi prefiero que no sea kontsumobide digamos como organismo público

hacer publicidad quizás engañosa de determinados productos financieros de determinadas entidades que no solo hacen los bancos producen esos productos financieros hay muchas más entidades que lo hacen como puede ser compañías de seguros e incluso cooperativas entonces cuando estamos hablando de esto y hablamos de

estén más protegidos también tenemos que tener cuidado y a lo mejor pensar que les estamos protegiendo

de esos bancos tan malos que queremos evitar que produzcan

el deterioro de la economía de los consumidores muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna

con el partido nacionalista vasco y a partir de ahí aclarar algunas cosas o puntualizar algunas cosas

importantes esta es una iniciativa que está en la línea de querer aplicar transparencia en un sector

que no es un sector más de la sociedad que no es un sector más de la economía que es un sector fundamental para el desarrollo

en mi intervención inicial he manifestado que desde la política nacional internacional se le ha dado mucho más apoyo

recurso económico a este sector que a la sanidad

que a las políticas sociales que incluso al empleo esta es una realidad de la sociedad economía de mercado en la que vivimos y por lo tanto

es evidente que no estamos ante un sector cualquiera sino estamos ante un sector que es

de la autonomía personal de la autonomía familiar de la capacidad de emprender de montar negocios de poder acceder a los bienes y servicios

que a veces como se suele decir te hipoteca durante toda tu vida por lo tanto no estamos hablando del chope ni estamos hablando de la aceituna

ni de ninguna frivolidad estamos hablando de algo que ha provocado a mí por lo menos me ha provocado como parlamentario

recibir a ciudadanos que han venido con problemas de desahucios

con problemas de abusos de confianza con problemas de cláusulas suelo es decir con problemas que les han llevado a la ruina

cuando adquirían un determinado producto que les ha llevado a quedarse en la calle que les ha llevado a quedarse sin empleo a mí me parece que eso tiene la suficiente seriedad incluso

la suficiente penalidad como para tratarlo con la finura que

un asunto de estas características no estamos ante cualquier problema no estamos ante un problema

o que no deba de merecer la atención de esta cámara

estamos ante un problema donde la relación entre el usuario y las entidades financieras es de desigualdad tremenda porque la mayoría de personas que adquieren productos

porque además como he dicho inicialmente casi siempre tienen que adherirse a lo que les pone la entidad financiera encima de la mesa

hay que hacer un gran ejercicio de transparencia hay que hacer un gran ejercicio de formación de ayuda a quien está usando estos productos que son los consumidores en ese sentido está hecha esta iniciativa una iniciativa que si tiene antecedentes como también lo he señalado en mi exposición inicial

no han cuajado lo suficiente y por eso efectivamente hemos querido ir un paso más allá y hemos querido plantear que a esta cámara en un plazo concreto nos traiga un trabajo en el que ver qué aporta en esa protección en esa información y en esa ayuda a los usuarios cuando utilizan los productos y los servicios

de cuál es el sector que se lleva en el país las

en la relación comercial entre el cliente y la entidad financiera y es el sector bancario además de una manera apabullante con unos crecimientos

tenemos ese problema y tenemos la obligación en defensa del interés público en defensa de los usuarios y además porque tenemos la obligación también de legislar en este sector porque es una competencia también de este parlamento vasco de las leyes que hace este parlamento vasco tenemos la obligación de implicarnos en esos problemas y de tratar de atenderlos

he tenido problema en que además pudiéramos añadir más en que pudiéramos añadir que

dijeran de dónde provienen sus beneficios y en qué aplican sus beneficios me parece bien pero ese es un asunto que

lo he tratado el señor lópez de munain sabe que he

a ver cómo estaba la correlación de fuerzas para poder aprobar esto y

me decían los diferentes grupos me llevaba a la conclusión de que podíamos hacer un debate como tantas veces en este parlamento para no concluir en nada y me parece que es algo frustrante en que aquí

y no vengamos a resolver no vengamos a avanzar aunque sea mínimamente aunque sea hoy menos de lo que uno quisiera pero algo más de lo que ya teníamos he hecho un cierto pragmatismo en esta propuesta

hoy podíamos darle una vuelta de tuerca a esto a lo que hemos traído aquí

y sin embargo ir más allá nos llevaba a salir sin nada

este asunto se resolviera con algo concreto muchas gracias

en su segunda intervención seguramente en el setenta por ciento de las cosas el problema

aprobó en aquel momento es porque no ha habido voluntad por parte ni del gobierno y en este caso kontsumobide no hizo realmente lo que se le pedía en este parlamento hizo otra cosa que era lo que sí seguramente estaban dispuestos a hacer pero no hizo nada más

todas las actividades que habían realizado toda la denuncia que se había realizado y las penas que se les habían impuesto a los bancos con lo cual esa proposición no de ley

porque no existe voluntad política de hacerlo ese es el mayor de los problemas

nada que vaya en contra de los intereses de los bancos

cuál será su nivel de consumo de revistas porno y si usted puede hacer

en bolsa o en cualquier producto financiero

lo que se planteaba para que usted lo pueda entender bien es que si de las ventas de esas revistas saca un beneficio

llega y diga voy a invertirlo en tal o cual otro fondo de inversión

porque con este fondo de inversión lo que se está invirtiendo es en

no le parecería ético que esa información se nos pueda dar a aquellas personas que vamos a invertir nuestros ahorros en ello ese es el quid de la cuestión eso es lo que se le puede pedir y se le debería pedir a los bancos un razonamiento ético ahora si usted quiere ridiculizar el discurso

a cualquier otra actividad económica que nos presenten qué van a hacer o de dónde han sacado sus beneficios dígame usted una actividad

empresas armamentísticas dígamela pero entre al debate no lo ridiculice

no el problema es que ustedes no hablan en contra de los bancos no es que habla en para los cinco banqueros el problema es que ustedes no son un peligro para los bancos pero los bancos sí son un peligro para la ciudadanía

los intereses de aquellos que desahucian los intereses de esos que ganan dinero

a través de la deuda externa a través de los espolios a través de los golpes militares en países democráticos eso es lo que ustedes están defendiendo

si no le he oído mal a tom clancy y encima para utilizar una frase de tom clancy al grupo de euskal herria bildu que algunos queremos hacer uso de la información porque la información es poder si es la misma persona si le he escuchado bien

declarado y defensor de las armas además con lo cual seguramente

que con el grupo de euskal herria bildu hoy estaría absolutamente de acuerdo con lo que defiende usted y con lo que usted

guerras porque la ética es lo que se echa de menos también en esta cámara eskerrik asko

yo no he venido a hablar hoy de desahucios ni otras cosas que puedan hacer los bancos hemos venido a hablar de si kontsumobide hace un estudio

y alguien además bildu en concreto metió en su enmienda una intencionalidad de hablar de los beneficios de si invierten en armas

o empresas automovilísticas o una multinacional me da lo mismo

yo estaría hablando de eso no obstante ya que

alguien que admiran ustedes o que al menos han trasladado aquí la admiración hacia él todavía la semana pasada nos explicó

y seguramente de una manera injusta no tengo ninguna duda

o no lo dijo sí lo dijo yo lo oí

pues nos estaba engañando pero eso es lo que dijo y no quiero yo decir con esto que

forman parte del sistema económico en el que vivimos todos por cierto también a los bancos se les va acorralando de alguna manera y hoy en día cada ciudadano que quiere hacer la mínima inversión de seis mil euros le obligan a hacer un test bastante complejo

si sabe dónde se mete si no sabe dónde se mete es decir sí algo se ha avanzado

de tal manera que ahora nadie puede decir que ha hecho una inversión y no sabía lo que hacía eso en principio

y aquí yo he venido a intentar explicar que vale que hagamos el estudio pero que por favor defendamos a los ciudadanos y a los consumidores vascos también de otras maneras por ejemplo insisto en las páginas web que hay grandes comparadores objetivos y neutros

ahí tenemos una información básica importantísima es decir yo he venido solo hablar de eso el resto lo podemos debatir

pues yo le conozco a tom clancy no le conozco en persona conozco lo que ha escrito no tengo ningún interés en conocerle

no sé porque ustedes por ejemplo tanta obsesión en el control y en la información

no le parece a usted esa intencionalidad de controlar hasta

no es una obsesión por la información un poco enfermiza y preocupante sin más

para ser libres para nada nos hace falta kontsumobide muchas gracias